la motivación de esta iniciativa tiene que ver con la importante marcha de jóvenes vascos fuera de nuestro territorio para poder buscar su futuro traigo a este parlamento un asunto que es de país un asunto que considero crucial en el país la fuga constante

de jóvenes de euskadi es uno de los problemas más importantes que tiene esta sociedad

comienzo solicitando aquí en este pleno que el exilio de las nuevas generaciones de vascos se aborde desde el rigor

cuestión sectorial de juventud sino que es una cuestión de fondo

determinante los datos a los que me refiero sobre los exilios de los jóvenes son

se está vaciando de jóvenes el país vasco tiene un problema grave

de menores de treinta y cuatro años y lo puedo demostrar ciento treinta y uno mil doscientos cincuenta y uno emigrantes menores de treinta y cuatro años

de entre dos mil y dos mil once esta cifra

de barakaldo de sestao y de berango juntos

y las jóvenes que se van cada año de euskadi equivaldrían a la desaparición de los municipios de arrigorriaga amurrio sopelana o elgoibar la realidad es que abandonan el país vasco cada año un número de jóvenes

actuales y esto es insostenible también demográficamente la proporción de menores de treinta y cuatro años en nuestra sociedad no hace

habiéndose reducido en términos absolutos desde dos mil a dos mil once

que se ven compensadas con la llegada de la inmigración según los datos del eustat a finales

sesenta y cinco años o más eso sitúa a euskadi dos puntos por encima de la media del conjunto de españa

además ciento tres municipios de doscientos cincuenta y uno el cuarenta y uno por ciento entre ellos bilbao barakaldo o donostia san sebastián tienen todavía

mayor demostrando su vulnerabilidad a la regeneración de sus barrios en la comunidad autónoma vasca se da una relación de uno coma cuatro personas de sesenta y cinco años o más

lo que rebasa el ratio de países europeos

del conjunto de españa que es del uno coma uno para acabar con los datos la población de euskadi a uno de enero del dos mil tres son dos millónes ciento noventa mil doscientos treinta

es el primer año en el que la población en euskadi aumenta y lo hace debido a la comunidad extranjera muy respetable

por eso estos datos son incontestables

por la juventud es un asunto a tomar muy en serio y que nadie se equivoque esto no es una consecuencia exclusiva de la crisis esto pasaba antes pasaba en bonanza económica

que se están marchando de aquí hace mucho tiempo lo han hecho también cuando había vacas gordas cuando la economía funcionaba y cuando había más empleo

es un problema de fondo y de país no es un problema coyuntural es un problema estructural digo que esta catástrofe demográfica que defino no es debido a la crisis ya que en los años dos mil seis por ejemplo

mientras euskadi pasaba a tener el segundo mayor per cápita en toda españa posicionándose en posiciones de crecimiento

en que más jóvenes marcharon del país vasco para buscar su futuro en otros lugares por tanto

y el menor paro también se está reflejando aquí

respeto al resto de españa y una sangría que puede poner en peligro

vasco al igual que el tejido socio familiar de los pueblos y de los barrios de euskadi entiendo

de este negativo fenómeno migratorio son la falta

y profesional y también las políticas de imposición y de estrechez y las consecuencias son especialmente graves como

en el futuro nuestro sistema de pensiones etcétera por eso para poder abordar este problema que defino hoy aquí para poder abordar la marcha de miles de jóvenes

al fondo de la cuestión hay que ir a cosas que van un poco más lejos que los consejos de juventud o las exclusivas políticas de juventud yo defiendo y el partido popular defiende una política global abierta alejada de sectarismos y de obligaciones de hablar de pensar o de vivir

al nacionalismo defendemos a los jóvenes que los jóvenes tengan expectativas libertades y que su posición es incompatible con cerrazón y con obligaciones

entendemos que hace falta menos separaciones menos imposiciones menos estrecheces y también hace falta más apertura más libertades personales para que la juventud vasca no desee marcharse de aquí cuando hay trabajo hace falta también más oportunidades

y la tranquilidad para poder vivir hace falta para todo ello que las políticas

en los y las jóvenes vascas no sean las políticas últimas del gobierno hace falta que esto sea una materia prioritaria señor lehendakari es crucial que los jóvenes vascos

y puedan regenerar la sociedad vasca por eso les propongo y proponemos la elaboración de un plan estratégico

de retención de los jóvenes y también con el fomento de la vuelta de los que están fuera para alcanzar esos fines esas medidas proponemos asuntos de empleo

un plan que debería elaborar el gobierno y ser mucho más amplio y ambicioso de las llamadas políticas de juventud también planteamos que se tramite la ley para que se ponga en marcha cuanto antes y queremos que sea una política prioritaria por parte del gobierno la política de la retención

a los jóvenes vascos esta iniciativa ha dado lugar a una enmienda que hemos firmado con el partido

su dedicación su interés por la cuestión y que considere como nosotros que los jóvenes vascos y sus posibilidades

que debe tener la política vasca les animo a todos a respaldar esta iniciativa que creo que es la primera que quiere abordar de fondo una cuestión tan importante como la de que ciento treinta y cuatro mil jóvenes

eskerrik asko decía maría del corral secretaria del estado español de emigración e inmigración

no está únicamente vinculada a la crisis que las y los jóvenes necesitan aumentar su experiencia y formación laboral

han decidido abandonar este paraíso terrenal en busca de nuevas aventuras

que pueden ustedes insultar a la inteligencia de la ciudadanía a la cara de la ciudadanía a la vez que la roban la expolian la desprecian la desahucian la humillan la empobrecen andrea fabra y su que se jodan

maría dolores de cospetal y su los votantes del pp sí pagan la hipoteca

cristina cifuentes y su la ley es muy permisiva y hay que modular el derecho de manifestación

y ahora nos vienen con una proposición para terminar con la fuga de jóvenes de la cav

como ya lo sabrán ahora mismo en la cav es del veintiocho coma siete por ciento estamos hablando que desde dos mil diez hasta el momento diecisiete mil jóvenes que se dice pronto diecisiete mil jóvenes han tenido que verse

ya que no han tenido ni tienen y con estas políticas neoliberales si no las atajamos ya tendrán futuro alguno en euskal herria por no recordarles

el estado que ustedes gobiernan el estado español el reino de españa que ahora mismo tiene un cincuenta y dos coma siete por ciento de tasa de paro juvenil saben cuánto tenía en el tercer trimestre del dos mil once justo antes de que ustedes accedieran a moncloa

pensar que ustedes campeones del mundo de destrucción y precarización del empleo puedan aportar tan solo una idea para

pero su propuesta estrella para desterrar el paro juvenil es premiar a los empresarios con reducciones a la cotización a la seguridad social

a cambio de reclutar a jóvenes sin experiencia para contratos a tiempo parcial relacionados con la formación pues bien

y en consecuencia a cobrar como si fueran trabajadoras y trabajadores ineptos que tienen demasiado que aprender y para ello premian a los empresarios que a partir de ahora podrán incrementar esas medias jornadas por la vía de horas extras la ganga del explotador

podrán por fin y a partir de ahora realizar contratos de formación gainera titulua jasotzetik kontratu bat sinatzeko bost urteko muga kendu duzue

los empresarios podrán enlazar un contrato de formación y uno de prácticas

joven trabajadora o trabajador mediante estas dos fórmulas absolutamente precarias de empleo en resumen

se libren de contratos indefinidos y obtengan bonificaciones y prebendas varias

máxima la verdad no tiene que doler señor barrio su modelo para evitar la fuga de jóvenes es someterlos a la esclavitud hacernos creer que la juventud solo puede acceder a un puesto de becaria o becario

porque las y los jóvenes nos vienen a decir ustedes con sus políticas que son gente poco preparada que tiene demasiado que aprender y que no tiene experiencia laboral

por eso tienen que pasarse media vida formándose y aprendiendo aprendiendo a ser sumisos aprendiendo a trabajar mucho y a ganar poco por no decir nada aprendiendo que señoras y señores del partido popular son ustedes la mano que les da de comer la mano que no deben morder

el reino de españa está gobernado por ninis unos ninis que ni estudian ni trabajan

y a recibir jugosos talonarios de consejos de administración de bancos y cajas amigas

órdenes impuestas por madrid para seguir contribuyendo a esa pobreza y a esa miseria juvenil

que no llevan a ningún sitio que están en beneficio de la patronal ya que no garantizan el cumplimiento de nuestros derechos básicos

de no doblegarnos ante las imposiciones de generar alternativas de cambio a pesar de las políticas absolutamente represivas y decididamente antijuveniles nuestra respuesta es la lucha porque es en donde ustedes más les duele y por eso vamos a salir a la calle por eso vamos a ir a la huelga general del treinta de mayo

empresarios banqueros y políticos corruptos que son una gangrena para nuestro futuro necesitamos la soberanía plena de euskal herria

sea absolutamente vinculante en todas las decisiones que nos ataña necesitamos políticas que verdaderamente incorporen la perspectiva de género y juventud a todas las áreas de actuación queremos decidir cómo trabajar y cuánto ganar queremos el respeto de nuestros derechos sexuales y reproductivos queremos una educación y una sanidad

queremos el reforzamiento de la cultura como motor de transformación social exigimos ser escuchadas ser realmente escuchadas

pero que a la hora de tenernos en cuenta para la elaboración de sus políticas

basta ya señoras y señores basta ya mientras tanto la juventud vasca precarizada además de criminalizada y perseguida

se cumple esa frase tan popular que dice que las y los jóvenes con estudios tienen tres salidas

pues bien les diré que algunas estamos esperando a que sean ustedes gobernantes ineptos

quienes se vayan cuanto antes lo más lejos posible ríanse pero es verdad eskerrik asko eskerrik asko

señorías permítanme que hoy en esta intervención en esta cámara no lo haga como miembro de sino como joven que soy

para dar voz en este parlamento vasco a tantos jóvenes que viven en euskadi a tantos jóvenes que han escuchado mil veces esa frase hecha de que los jóvenes somos el futuro pero que no vemos los hechos que la acompañan a tantos jóvenes que nos han alagado los oídos diciendo que somos la generación mejor preparada

porque el acceso de una vivienda asequible parece un privilegio de unos pocos

a tantos jóvenes que ven retrasados su proyecto de vida porque la conciliación de la vida familiar y laboral se empieza a atisbar ahora

para que conozcamos realmente cuáles son sus problemas y podamos plantear soluciones hoy antes de entrar en el debate en sí de la proposición no de ley me gustaría compartir con todos ustedes una reflexión personal se piensa habitualmente

corresponde a los adultos y que el futuro nos corresponde a los jóvenes pero creo que mediante

lo que se intenta realmente es poner restricciones a las generaciones jóvenes intentando evitar que interfiramos en los asuntos serios de la vida social actual y que pospongamos la realización de nuestros sueños ideales

hasta cuando llegados a adultos nos hayamos olvidado de todos ellos

es por esto que hoy comienza a rechazar la afirmación de que el futuro pertenece a los jóvenes porque es una afirmación conservadora

y la creatividad de los jóvenes pues toda iniciativa y toda acción creativa para existir debe de realizarse en el presente mientras que si la relegamos al futuro corre el riesgo de permanecer

o que no ocurra nunca por eso los jóvenes estamos cansados de parches de planes puntuales de políticas de juventud construidas a remolque

que den de verdad soluciones a los problemas y respondan a las necesidades que tenemos la juventud en estos momentos

es una etapa desafiante conflictiva e importantísima en la evolución madurez y en el equilibrio personal

si a todo esto le sumamos el entorno en el que nos desarrollamos un mundo globalizado

pero sobre todo anticipada y no lo estamos siendo por eso desde el grupo socialista vascos creemos que la solución comienza

en el que se incluyan posibles medidas para solucionar los distintos problemas que sufrimos los jóvenes entre ellos cómo no

pero creemos que ya es hora de que esta cámara logre un consenso para la aprobación de una vez por todas de una ley vasca de juventud y necesitamos para ello que el gobierno vasco remita lo antes posible para su tramitación parlamentaria dicha ley

que tenía dieciséis proyectos de ley para esta legislatura no estaba la ley de juventud la verdad que como joven me siento triste y apenado de que su gobierno no crea en nosotros y no solo es que lo pide el partido socialista

en el cual también hacía esa referencia de que euskadi necesita una ley vasca de juventud ese debe ser el camino señorías porque no solo nos debemos de preocupar por los jóvenes que desgraciadamente se ven obligados abandonar euskadi sino también de los jóvenes que se quedan aquí

en euskadi no solo porque como presenta la enmienda del partido nacionalistas vascos

en la sanidad en el ocio en la formación y en la educación quiero aprovechar este momento que se me brinda para trasladar mi apoyo

para manifestarse a favor de una educación pública de calidad porque ya va siendo hora señorías de que euskadi mire de frente a sus jóvenes para darles soluciones

es en el potencial y las posibilidades que tiene la juventud vasca pero para explotar todo ese potencial hay que ser coherente con las políticas que ponemos encima de la mesa hay que dotar de recursos y dar oportunidades

los jóvenes llevamos mucho tiempo demandando actuaciones concretas por parte de las administraciones para que de una vez por todas

y que en estos momentos somos los jóvenes el sector de la población que peor lo está pasando con esta crisis económica

todos los informes y todos los estudios por eso las instituciones deben de procurar encontrar soluciones para mejorar el presente pero también para garantizar nuestro futuro me gustaría también aprovechar para hacer un llamamiento a esos jóvenes que creyendo ser el futuro esperan con ansias la llegada del mañana prometedor planificando

sus creencias sus convicciones tan solo por esperar el mañana a ellos me quiero dirigir pidiéndoles que dejen de estar equivocados que cambien la actitud

hoy a los jóvenes es tan valioso el tiempo es tan corto nuestro pasar que no tenemos que perderlo esperando lo que pasará mañana el futuro se construye actuando

en los órganos de que toman las decisiones es verdad que todavía somos

pero eso no quita para que la juventud sea la que abra los ojos a la administración señorías nosotros los jóvenes no somos el futuro del país

construyendo el futuro de euskadi no se olviden muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna

entzundakoak entzunda hemos oído muchas cifras

según el señor basagoiti euskadi se está vaciando de jóvenes en absoluto pretendemos restar importancia a este fenómeno pero para situar este debate queremos aportar datos y conclusiones de un análisis de los movimientos migratorios de la juventud vasca elaborado por el observatorio vasco de la juventud

la mayoría de las personas jóvenes que salen de euskadi tienen nacionalidad extranjera en la última década la tasa de retorno desde el extranjero de la juventud nacida en euskadi

el observatorio vasco de juventud ha realizado un análisis de los movimientos migratorios de la juventud vasca a partir de la información de la estadística de movimientos migratorios del eustat el saldo migratorio del tramo de edad de dieciocho a treinta y cuatro años es positivo en la cav según la estadística de migraciones del eustat son más los jóvenes que llegan a la cav que los que se van

está protagonizada por personas jóvenes nacidas en el extranjero que vuelven a sus países de origen o a otros destinos fuera de españa por ejemplo

de los cuales solo quinientos noventa y tres corresponden a personas nacidas en la comunidad autónoma de euskadi

enplegua eta jarduera ekonomikoa aipatzen genituen gure hiru helburu nagusien artean en aquel documento nos comprometimos a desarrollar programas orientados a la creación directa de empleo y en particular programas de acceso a una primera oportunidad laboral para la juventud vasca en el debate de investidura

estableció como prioridad del gobierno la defensa del empleo existente de las condiciones y los estímulos precisos para la generación de nuevos empleos el primero de los compromisos programáticos que presentó ante esta cámara fue el relativo a un plan por la reactivación económica y un plan de choque por el empleo anunció que el primer compromiso de gobierno se centraría en lo prioritario

y anticipó que presentaría una propuesta que incluyera cinco áreas de actuación el apoyo a las personas emprendedoras y a los profesionales autónomos el impulso a la innovación

este gobierno pondrá en marcha un plan de reactivación del empleo con el objetivo de paliar los efectos negativos de la destrucción de empleo producida en euskadi como consecuencia de la crisis

desfavorecidas serán los principales ejes de actuación martxoaren zortzian legebiltzar honetan egindako enpleguari buruzko pleno monografikoan

el programa se encuadra en las líneas básicas y en las decenas de propuestas de resolución aprobadas

parlamento en el pleno monográfico de empleo

muchas gracias presidenta buenas tardes a todas y a todos

popular se muestra preocupado porque los jóvenes abandonen euskadi y plantea para que no se marchen más de los que ya se han ido y vuelvan los que se marcharon una serie de medidas que nosotros en todo caso consideramos parches no digo que no sean un intento más o menos bienintencionado pero en nuestra opinión son claramente parches así el grupo popular

un plan estratégico euskadi joven con dos ejes de acción para la retención de jóvenes y para el regreso de los que se fueron

un fondo de lucha contra el desempleo juvenil por su parte eh bildu planteaba un plan integral de juventud

el desarrollo del tercer plan joven de euskadi dos mil veinte y la puesta en marcha la aprobación de la ley vasca de juventud y finalmente el grupo nacionalistas vascos la puesta en marcha de un plan de empleo ya digo medidas todas ellas que pueden ser consideradas interesantes pero que son claramente

insuficientes y por lo que veo tampoco han sido ustedes capaces de ponerse de acuerdo sobre qué es exactamente lo que deberíamos hacer para solucionar este grave problema nosotros tenemos una opinión sobre las razones por la cuales los jóvenes españoles

al conjunto de los jóvenes españoles están desesperados tenemos una opinión sobre las razones por las cuales a día de hoy los jóvenes españoles están

la ruina económica provocada por el partido socialista obrero español y el partido popular durante los últimos años esta es la razón fundamental por la cual

en el año dos mil trece están desesperados las políticas del partido socialista obrero español y del partido popular en el conjunto de españa han provocado

el incremento de la desigualdad el incremento de la pobreza la dificultad de encontrar un trabajo la imposibilidad de encontrar un trabajo digno contratos precarios contratos basura sueldos miserables reformas laborales contraproducentes e injustas falta de esperanza en el futuro desesperanza hartazgo y un largo etcétera bien todo esto

las políticas disparatadas y fracasadas impulsadas por el gobierno central por parte del partido socialista obrero español y por parte del partido popular ya digo todo esto por las políticas aplicadas por el pp

sus intereses partidarios a los intereses de los ciudadanos negándose permanentemente a impulsar los cambios que el país necesitaba y necesita

sus intereses sectarios es decir el partido popular y el partido socialista obrero español durante largos años han antepuesto sus intereses de partido a los intereses de los ciudadanos y el resultado es el que es la ruina del país y la desesperanza de los jóvenes en este caso de los jóvenes españoles además

han arruinado y saqueado las cajas de ahorros luego rescatadas

en la que ahora nos encontramos por la mañana la señora llanos hablaba de la relación entre los partidos políticos

ahora podríamos hablar de la relación entre los partidos políticos y las cajas de ahorros para utilizarlas y saquearlas lo cual a provocado la ruina económica del país

para buscar un empleo esto también es cierto y esto hay que decirlo y nosotros obviamente décimos todo esto sin faltar el respeto a nadie pero conviene decirlo y tenemos la corrupción política en el conjunto de españa y tenemos también la corrupción política generalizada

un aliciente para que nuestros jóvenes decidan quedarse y la ausencia de medidas concretas y contundentes para luchar contra esta lacra y ahí el partido socialista obrero español y el partido popular tienen mucha responsabilidad pues bien estas políticas han llevado al país a la ruina y a los jóvenes

ahí están los datos un veintisiete por ciento de desempleo un cincuenta y cinco por ciento de paro juvenil más de dos millónes de familias sin ingresos

de euskadi efectivamente también se han marchado jóvenes durante los últimos años ahí están los datos señalados por el grupo popular en su iniciativa algunos otros datos que ha apuntado el señor basagoiti y algunos otros datos que podríamos añadir

en dos mil doce por diversos motivos entre ellos el laboral o la tasa de paro actual

o entre los jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años un veintisiete por ciento aunque la situación en euskadi lleva años siendo claramente mejor en lo económico también de aquí se han marchado miles de jóvenes económica y de falta de oportunidades laborales podemos añadir alguna otra principalmente durante décadas durante largos años el terrorismo de eta de las políticas nacionalistas incluida por cierto la política de imposición lingüística desarrollada durante décadas por diferentes gobiernos nacionalistas y no nacionalistas muchos jóvenes vascos se han tenido que ir por estas razones por lo tanto

para que miles de jóvenes vascos se hayan ido en los últimos años de euskadi variadas razones económicas y otra serie de razones como el terrorismo de eta o las políticas nacionalistas también por esto se han ido miles de jóvenes de euskadi en los últimos años por lo tanto están bien los planes de empleo que ustedes quieran plantear

todos los planes estratégicos que ustedes quieran y que se apruebe la ley de juventud cuanto antes estará bien pero es claramente insuficiente por eso decía al principio que son parches lo cierto es que en el conjunto de españa o en euskadi mientras las políticas económicas que se apliquen sigan siendo las mismas que hasta ahora los jóvenes carecerán de esperanza y buscarán siempre

mejor por lo tanto las medidas para que los jóvenes no huyan del lugar donde viven ya digo esto vale para españa y vale para euskadi es impulsar todas las medidas políticas económicas y sociales necesarias

incluyendo la apuesta por las nuevas tecnologías incluyendo la apuesta por la innovación por los sectores emergentes

y un cúmulo de políticas integrales y globales para modernizar euskadi y salir de esta situación cuanto antes pero lo cierto es que el partido popular

a la ruina y en euskadi aún siendo la situación

lo cierto es que los jóvenes y los no tan jóvenes han sufrido además la presión nacionalista y el terrorismo de eta por lo demás cabe decir

que los jóvenes marchen y se formen y conozcan mundo todo lo contrario es muy positivo efectivamente el problema es cuando la situación económica o social les obliga a ello y esta situación económica y social debe y puede cambiarse obviamente

hasta ahora con políticas integrales y globales integrales y globales protagonizadas también por los propios jóvenes por lo tanto y esto vale para españa y para euskadi para que los jóvenes no se nos vayan

hacer del país o de la comunidad autónoma un lugar agradable donde vivir

incentivar la actividad económica ofrecerles oportunidades poner las condiciones para que puedan desarrollarse laboral y vitalmente y esto se logra con políticas integrales y con políticas globales no con parches

profundos y esto es lo que nosotros hemos venido defendiendo durante los últimos años y creo que es lo necesario aunque la tarea lógicamente es difícil para frenar esta sangría desesperada de jóvenes desesperados que marchan de euskadi o de españa buscando un lugar mejor donde vivir

eskerrik asko presidenta andrea yo he venido a este pleno a este punto y

un problema crucial que es el problema de los jóvenes que se marchan de euskadi

por incomodidad no por buscar nuevos campos no por conocer otros lugares porque así les apetece sino porque euskadi no les ofrece las alternativas ni vitales ni personales ni sociales

un debate que creo que es importantísimo no hay sociedad que se precie y quiera tener futuro la mayoría de sus jóvenes o una parte muy importante los últimos datos de la encuesta

de la población joven que se va de euskadi

las personas más y mejor formadas aquellas en las que más hemos invertido en formación aquellas que deberían liderar el progreso económico y social de nuestra tierra en los próximos años por lo tanto

yo lo ponía aquí esta tarde encima de la mesa como un problema crucial y qué me he encontrado me he encontrado a un partido nacionalista vasco que niega los datos de raíz que niega el problema

serán los suyos los que no se van el resto de la juventud vasca muchos de ellos

maneiro es el discurso de la demagogia extrema

pero cómo se puede defender en una cámara seria que los partidos como el pp

somos unos partidos que tenemos la culpa de todo de esto lo mal que está pasando los jóvenes pero vamos a ver seamos sensatos

si su líder lleva treinta y cinco años subido al coche oficial y aún no se ha bajado

de parlamento de gobierno de eurodiputada y ahora vienen dando clases de regeneración y de que la política es como algo malo y lo hacen mal todos

o sino podría recordar que esas políticas de imposición que han hecho que

son también políticas votadas apoyadas y aprobadas en el gobierno de la líder del upyd por lo tanto dejemos la demagogia vayamos al fondo

que son los jóvenes ahí señores y señoras del pnv

que los datos son concluyentes según el eustat cuando no había crisis cuando no había rajoy cuando había crecimiento económico en el dos mil se fueron nueve mil seis jóvenes

en el dos mil dos diez mil ciento diecinueve en el dos mil tres

y todos esos se están yendo cuando hay bonanza económica cuando no hay ese tipo de contratos que dicen algunos cuando no se hace esa política que ustedes aquí quieren satanizar cuando euskadi va bien

algo muy mal estamos haciendo por eso yo les propongo y les pongo encima de la mesa en este caso una enmienda pactada con el partido socialista para que empiece a colocarse como prioridad la política de los jóvenes y para los jóvenes

yo es que si fuera lehendakari lo que haría es que cualquier iniciativa de gobierno tendría en cuenta la perspectiva de los jóvenes teniendo en cuenta que

y que es crucial que los jóvenes vascos puedan tener las expectativas de vivir en el país me he dejado para el final la intervención

la representante de eh bildu pero reconozco que la intervención de la representante de bildu

nos ha enseñado que la presidenta de este parlamento deja insultar no criticar insultar

bai sigo entonces se puede insultar pero yo no voy a ser como ellos encima

a este pleno a insultar a intentar agredir verbalmente y encima

querrán que les demos las gracias o que les aplaudamos

y antes nos tiraban cócteles molotov pero yo no les voy a dar las gracias eskerrik asko

señor basagoiti lo que a ustedes les molesta es que digamos verdades como puños esto que le he dicho yo

no tienen la opción de decírselo y hago yo de canal de comunicación

los campos de forma permanente y en base a sus necesidades y aspiraciones

hacer una oferta que garantice la satisfacción de las necesidades de todas y todos la juventud debe ser soberana en todos los aspectos consiguiendo capacidad de decisión y desarrollando sus propios modelos trabajaremos para destruir este sistema construido en favor de los mercados y del capital

para ello es indispensable que desde ya mismo se den los primeros cambios en nuestros modelos de vida y en nuestras filosofías para que la solidaridad el reparto del empleo y de la riqueza para que la igualdad de oportunidades y el reparto del trabajo para todas las personas sea el valor que nos una

para poder realizar todos los cambios que proponemos planteamos la elaboración de una ley vasca de juventud dicha ley deberá garantizar que se pongan en marcha las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la juventud

la ley establecerá los mínimos para satisfacer

vasca integrando unos derechos que bajo ningún concepto se podrán vulnerar la elaboración de esta ley debe comenzar con un amplio diagnóstico de la juventud vasca para saber su realidad actual una vez seamos conocedoras de la problemática y hayamos identificado las necesidades y carencias que existen

elaboraríamos la ley mediante un proceso participativo de interlocución directa con el consejo vasco de la juventud y demás agentes y organizaciones juveniles vinculando

apostamos por el desarrollo con carácter urgente de un plan integral de juventud que nos proporcione todas las garantías necesarias para que la transversalidad de género y juventud esté

todas las propuestas concretas para el beneficio de la juventud vasca en materia de derechos sexuales y reproductivos vivienda educación sanidad cultura euskera movilidad entre otras

generalidad nos decía la señora berriozabal generalidad treinta años después

treinta años y no tenemos una ley vasca de juventud respondan a eso o qué van a decir en gipuzkoa más no señora no hay argumento para hablar que tras treinta años de juventud no tenemos una ley que vele por la garantía de nuestros fundamentales no hay nada más que decir

muchas gracias señora presidenta y muy brevemente mi turno de réplica

hablando del plan de empleo que propone el gobierno y de temas de emancipación y se atreve a decir que los socialistas con nuestra enmienda a la totalidad es huir del problema quién huye del problema señora berriozabal

una ley vasca de juventud el partido socialista lo que tiene muy claro es que hay que atajar el problema de raíz

que tenemos más problemas y no podemos tener un gobierno vasco que mire a otro lado y que no nos dé soluciones atajemos el problema de raíz y por eso hemos presentado esa enmienda por eso hemos llegado a un acuerdo

un plan donde se desarrolle por parte del gobierno que ya lo ha dicho la consejera en la comparecencia que tuvimos que ellos están de acuerdo con ese plan desarrollar en el cual se puedan tomar medidas para paliar ese efecto que estamos sufriendo los jóvenes de migración forzosa y que acaban yéndose al extranjero a buscar empleo pero también necesitamos esa ley esa ley

que entre los dieciséis proyectos que estaban no la quiere traer y que el consejo vasco de la juventud que tanto ustedes apoyan lo pide también que no solo lo pide el partido socialista y hoy lo ha dicho

la asociación de jóvenes vascos entonces yo lo que pediría a esta cámara es que nuestra enmienda porque es así como se comienzan a hacer las políticas de juventud

querría dar las gracias al señor basagoiti porque usted en su primera intervención ha pedido rigor y seriedad en el debate de esta proposición no de ley no comparto a lo mejor el tono de la señora representante

comprende usted que tengamos que escuchar a compañeras de su partido como la señora esperanza aguirre decir que es un motivo de optimismo que los jóvenes se vayan fuera al extranjero a buscar trabajo cómo podemos escuchar

decir que nos vamos por espíritu aventurero cómo podemos escuchar a la ministra decir hablar de movilidad exterior cuando es una migración forzosa

que tenemos que rezar a la virgen del rocío para salir de la crisis y generar empleo no me sorprende y se lo agradezco

pero y la última la de hoy la de que salió ayer en televisión española que decía

poner velas en altares reducía la ansiedad de las personas que están en desempleo

así que yo le agradezco el tono pero pido por favor que se apoye la enmienda de totalidad que ha presentado el partido socialista y que ha llegado a una transacción

para que de una vez por todas en euskadi tengamos una ley vasca de juventud gracias eskerrik asko zaballos jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den berriozabal andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburua diez mil seiscientos

señor basagoiti el pnv no elabora ninguna estadística no lo hacía antes y tampoco lo hace ahora lo único que hace es

del observatorio vasco de la juventud si quiere luego se los dejo y usted se los estudia batzuk joan eta besteak

somos conscientes de que la salida actual de la crisis económica

un adecuado equilibrio entre la política de austeridad presupuestaria y la política de estímulo

por eso entendemos que es un programa necesario y que trata de dar respuesta a la delicada situación que está viviendo

este programa de choque es solo un primer paso y tiene un impacto a corto plazo y si ustedes se han molestado en analizar el programa de reactivación de empleo sabrán que en el anexo dos se enumeran todas y cada una de las propuestas de resolución aprobadas aquí mismo el ocho de marzo también las que todos ustedes propusieron

y estableció un trabajo para varios años y el gobierno lo va a seguir

aritzeko estaba previsto que este debate se hubiese

en dos ocasiones por un momento creí que después de tanta

la iniciativa principalmente por dos motivos por un lado porque usted sabe perfectamente que el gobierno ya ha elaborado un plan de empleo que contempla lo que usted

y que su propuesta ha perdido todo el sentido que podía haber tenido

ha renunciado a todo lo que pedía para asumir la enmienda del partido socialista en su totalidad

con la actitud del gobierno estatal ni con la que lleva a cabo su partido y el señor zaballos comparto con usted la necesidad de elaborar un tercer plan joven

que entendemos que es necesario disponer de una herramienta como el plan pero permítame que le diga que ustedes los socialistas no son los más indicados para exigir al menos con tanta vehemencia un plan y una ley de juventud y me explico porque ustedes fueron los que dijeron que elaborarían al mismo tiempo un plan y una ley de juventud

el plan estaría aprobado y el proyecto de ley pasado por el consejo de gobierno le recuerdo que únicamente elaboraron un marco de referencia del plan joven pero hay más y ahora que hablamos tanto de calendarios legislativos ustedes trajeron un proyecto de ley con un año de retraso proyecto

cuando apenas faltaban unos días para comenzar la campaña electoral de las municipales y forales y otro de los conceptos de hoy

proyecto que solo les gustaba a ustedes que no consiguió apoyos en esta cámara ni siquiera del partido popular que entonces era su socio preferente y por no repasar las críticas y observaciones que realizaron la egk y la cojua entre otros

el señor basagoiti y su gran obsesión upyd y su segunda gran obsesión

allá donde está el señor basagoiti en la tele en la radio allí va con el asunto rosa díez y con el asunto upyd

ha dedicado más de la mitad de su intervención en responder al único grupo que ni siquiera había planteado enmienda más de la mitad de su intervención centrado en descalificar las cosas que yo he planteado

más de la mitad está usted obsesionado conmigo con upyd y con rosa díez relájese no se preocupe usted relájese y escuche y escuche las verdades que se le dicen y escuche las verdades

de demagogia extrema únicamente por relatarlas por decir que el partido popular y el partido socialista obrero español lógicamente son responsables

a la ruina ustedes y ustedes son los responsables los máximos responsables de la situación en la que se encuentra el país quién es el responsable si no

no son verdad los datos que yo he dado veintisiete por ciento de paro

cincuenta y cinco por ciento de paro juvenil mas de dos millónes de familias sin ingresos cajas de ahorros arruinadas y saqueadas por los partidos políticos

recordemos el caso bankia y tantos otros esto no es demagogia extrema esto es el resumen de lo que ustedes y ustedes han hecho en los últimos años llevar

aportación cajas de ahorros arruinadas y tomadas por los partidos políticos

a cuenta de los ingresos de los ciudadanos esa es la realidad una justicia tomada por los partidos políticos y miles y miles de desahucios

durante largos años esto no es demagogia extrema esta es la realidad y la culpa de todo esto no la tiene el único escaño de upyd

rosa díez que llevará al menos quince años sin coche oficial pero usted allí a donde va

etb todas las televisiones no esos son escoltas

lleva más de quince años sin coche oficial y por lo tanto no falte a la verdad y concéntrese concéntrese en lo que ustedes han hecho durante

especialmente el último año y medio han llevado a la ruina al país y han hecho que miles de jóvenes españoles

porque han perdido la esperanza esto es lo que yo le he dicho con todo el respeto y creo que esto es un hecho cierto

le he dicho en todo caso señor basagoiti si tiene usted la receta mágica para impedir que los jóvenes marchen del lugar donde viven porque en el lugar donde viven no hay trabajo se encuentran incómodos y no tienen esperanza

esa receta que usted tiene y que aquí ha planteado alguna cosa planteásela al señor rajoy

para ver si hace algo positivo y si no es capaz de hacer algo positivo y detener esta sangría

que se vaya esto es lo que yo creo que debería hacer en lugar de hacer demagogia barata gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias presidenta con esta iniciativa proponemos que

inste al gobierno vasco y al resto de instituciones implicadas a abandonar definitivamente el proyecto de construcción del puerto exterior de pasajes por ser lo que

socialmente innecesario medioambientalmente insostenible y económicamente inviable a que estudie otras alternativas que posibiliten la regeneración de la bahía

compatibilizar las actividades portuarias con los usos sociales y el respeto al medioambiente en este sentido se recabará colaboración a los puertos de bilbao y baiona

de esas infraestructuras y poder así mejorar la oferta y finalmente a impulsar la regeneración

sin condicionarla a la hipotética construcción de una dársena exterior lo cierto es que las noticias y las informaciones acerca del puerto exterior de pasajes digamos que

para pedir que se abandone definitivamente esta macroinfraestructura surgen nuevos argumentos surgen nuevas voces que piden

este proyecto se abandone cuanto antes lo último que hemos leído es que francia ha emitido un dictamen desfavorable sobre el puerto exterior de pasajes y que el plan director

acaba de recibir quinientos noventa y nueve alegaciones en ese país lo último que hemos leído es que las autoridades francesas advierten de los riesgos que esta infraestructura podría ocasionar sobre el medio marino los recursos pesqueros

en el sur de francia lo último que hemos leído es que la oposición de francia es total vistas las alegaciones que se han presentado durante el período de consulta pública

de nueve folios que recoge las principales inquietudes que han formulado

de infraestructuras del puerto de pasajes la comisaria arrieta

ha sido la encargada de formular el dictamen final de la consulta realizada en francia

de dos mil doce y el veintiocho de enero de dos mil trece entre las dudas la señora arrieta se pregunta si el puerto exterior sería compatible con el proyecto de corredor ecológico marino previsto entre san sebastián y biarritz que es obvio que no

sobre la sincera evaluación de los costes su viabilidad en plena crisis y el verdadero estudio de todas las opciones existentes los franceses consideran poco riguroso que se pretenda construir un puerto que mueva diecisiete coma cinco millónes de toneladas en dos mil treinta cuando en dos mil tres esa cifra era de seis millónes y en la actualidad de tres coma uno y se preguntan por qué no se ha valorado suficientemente la opción de colaborar con el puerto de bilbao

que aún podría aumentar en doce millónes de toneladas su capacidad de tráfico de mercancías la comisaria enumera los principales riesgos que causaría la futura dársena de pasajes

y contra aves migratorias en fin en francia saben lo que aquí también sabemos nos encontramos ante una herejía medioambiental social

esto lo han dicho cargos públicos de toda condición diversos colectivos de ecologistas asociaciones vinculadas con la naturaleza el sector de la pesca

también en euskadi hay una posición contundente cada día mayor a este despropósito los propios partidos políticos vascos que antes apoyaban el proyecto ahora guardan silencio y quienes incluían en sus programas electorales su apoyo

ahora lo borran de sus programas en fin hemos numerosas ocasiones la inviabilidad evidente del proyecto es un proyecto socialmente innecesario medioambientalmente insostenible y económicamente inviable datos hay miles para sostener esto que digo ustedes manejan los mismos datos que un servidor por lo que de lo que se trata y nosotros queremos es que definitivamente

haya defendido en el pasado este parlamento diga que se decide a abandonar este proyecto por inviable insostenible e innecesario por ser un dislate en definitiva y que cuanto antes se pongan en marcha todas las actuaciones necesarias para regenerar la bahía todas las actuaciones para hacer viable

y todas las actuaciones necesarias para activar la reforma urbanística de uno de los entornos más degradados de euskadi ya digo razones hay miles para defender esta

no de ley razones medioambientales razones sociales razones económicas el monte jaizkibel es un lugar único y de gran belleza un lugar peculiar y extravagante por su geología formaciones semejantes a las que acoge solo las podemos encontrar en australia hablamos de una zona marina de gran diversidad

con la construcción del innecesario puerto exterior

mientras que francia algo más allá sí que efectivamente la protege hablamos de praderas de algas rojas

de un espacio con una riqueza excepcional de fauna y flora hablamos de joyas geológicas en los acantilados del monte de jaizkibel

obviamente hay que tratar de conciliar siempre el cuidado del medio ambiente y el progreso económico pero es que en este caso

construir el puerto exterior perjudica el medio ambiente y perjudica también el progreso económico es por lo tanto innecesario

hace imposible que se puedan generar recursos suficientes para sufragar los costes la demanda del tráfico de mercancías sigue cayendo y la devaluación de los suelos restaría rentabilidad

los sindicatos portuarios también rechazan el proyecto el proyecto no es rentable solo tendría una rentabilidad del cero coma veinte por ciento sobre los capitales invertidos

la vigente ley de puertos la fórmula de financiación es jurídicamente inviable una fórmula basada en la supuesta venta de los terrenos del actual puerto a un conglomerado

es ciertamente un dato falso porque no se incluyen aquellas inversiones necesarias para conectar el nuevo puerto con las redes de carretera y

el puerto actual se mueve en cifras de tráfico de mil novecientos sesenta y siete

es no caer más los sindicatos han denunciado que durante los últimos años los presidentes del puerto se han dedicado a negar el potencial real del puerto actual gastando el dinero y las energías en el proyecto del puerto exterior buscar nuevos tráficos que compensen la pérdida de actividad del puerto actual en fin las previsiones de tráficos e ingresos para el nuevo puerto son inverosímiles el cuento de la lechera y por decirlo gráficamente no hay barcos por ahí en espera de ser captados no hay barcos haciendo cola en las afueras del puerto que quisieran entrar a este nuevo puerto por lo tanto no hay demanda además no tiene sentido impulsar este puerto cuando ya existen puertos cercanos con los que por cierto no podría competir

construir un puerto exterior en gipuzkoa para hacer competencia al puerto de bilbao

y un disparate no puede ser que se pretenda construir el puerto exterior de gipuzkoa para nada más y nada menos que hacer competencia al de bilbao

bilbao y baiona buscar sinergias sumar en lugar de dividir colaborar en lugar de enfrentarse o tratar de hacer competencia por motivos territoriales hay que centrarse en hacer que el puerto actual funcione modernizarlo

esta es por lo tanto la proposición no de ley que nosotros traemos a esta cámara

que sirva para el debate y para que el resto de partidos políticos muestre su posición y su opinión actual sobre la materia

antes que defendían hace años o que defendían hace un mes al menos sirva por lo tanto para que cada partido político se retrate y opine sobre esta cuestión que a nosotros nos parece

muchas gracias señora presidenta el puerto de pasaia es una empresa de las más importantes de gipuzkoa en cuanto a la creación de empleo directo e indirecto la generación de riqueza y el compromiso con el entorno y con las personas

pero además es importante destacar que el tráfico de mercancías del puerto de pasaia está dirigido a la industria gipuzcoana es una pieza fundamental de su desarrollo los tráficos más destacados en el puerto de pasaia son los productos siderúrgicos

tráfico procedente de navarra y aragón pero también destaca el crecimiento de los tráficos de automóviles papel y pasta de madera sobre otros tráficos a través de pasaia llegan a nuestras empresas por ejemplo papeleras y las siderúrgicas del territorio sus materias primas sus productos ya elaborados y si no existiese el puerto de pasajes cerca de sus fábricas muchas de estas empresas tendrían problemas ya que sus costes de producción se dispararían al incrementarse el coste del transporte pasaia es por tanto

etcétera a veces cuando se comparan las cifras globales parece que otros puertos como el de bilbao

pero cabe destacar que una gran parte del tráfico de bilbao se debe al movimiento de gas y petróleo y al de mancontenedores materiales que en pasaia por su actual ubicación no se pueden manejar

que ha respondido y responde a las necesidades y características del tejido económico guipuzcoano y que por tanto deberá adaptarse a su evolución para seguir prestando el mejor servicio a todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas ya que solo

por tanto y por decirlo más claramente los buenos resultados del puerto de pasaia se traducen en un buen síntoma de mejoría guipuzcoana el actual puerto sufre una serie de debilidades

como por ejemplo los altos costes portuarios para los operadores son los costes más

salvo ceuta y melilla también como debilidades tienen las limitaciones físicas o las carencias estructurales y no lo décimos los socialistas los presidentes de la dársena durante las últimas legislaturas y la asociación del puerto giport dicen que la falta de espacio

que protagonizan el tráfico marítimo en la actualidad lo que deja a pasaia

por eso el puerto exterior al que el partido socialista sigue apostando

como el incremento del tráfico de automóviles o de productos petrolíferos contenedores tráfico ro ro y otros tráficos consolidados en puertos cercanos y no podemos negar que la construcción del puerto exterior va a permitir la liberación de superficie del dominio público marítimo terrestre

con la siguiente eliminación de la barrera arquitectónica que actualmente separa pasai antxo del resto así como la renovación integral urbana y mejora de la calidad ambiental en la bahía

el aumento generalizado de la calidad de vida de la población residente en la bahía nuevas actividades alejadas a dos coma cinco kilómetros nuevas áreas residenciales con accesibilidad con el tráfico desde la nmenos uno y de la ap ocho incremento de la intermodalidad transvasando el ferrocarril

por eso las instituciones no debemos mirar para otro lado porque si el puerto exterior no se realiza se imposibilita

por nuevas ocupaciones el actual puerto de pasaia se queda viejo y por tanto existe la posibilidad de que la pérdida de tráfico se haga continua por traslado de tráficos a otros puertos sin limitaciones estructurales lo que conllevaría la inviabilidad del puerto actual se va a producir

podría darse una deslocalización de las industrias a otras zonas geográficas por el incremento de los costes logísticos pero como empresa importante que es el puerto de pasaia debe pensar en el futuro de sus servicios y también

y las personas así durante la pasada legislatura se ha venido realizando importantes avances

se han construido nuevos pabellones que suavizan las molestias

los comercializadores y consumidores se han mejorado accesos amarres pero los vecinos del puerto tanto los de pasaia errenteria etcétera se merecen más y los clientes del puerto el goierri y tolosaldea también

condicionadas por el puerto y las empresas puedan obtener a través de este puerto al mundo acceso a cualquier lugar del planeta

con rigor y transparencia en el puerto exterior de pasaia no vamos a utilizar palabras como estratégico

con la construcción del puerto exterior de pasaia solo entonces podrá iniciarse la verdadera regeneración de la bahía

durante tantos años nos han venido dando el entorno de la bahía de pasaia es un espacio complejo

existen problemas sociales urbanísticos y económicos pero también es un espacio lleno de oportunidades

y mejorar sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes pero además

y su actividad logística de transporte incide en más de cien mil puestos de trabajo en toda gipuzkoa

diálogo acuerdo y coordinación entre instituciones esa es la clave porque esta infraestructura es un elemento tractor y necesario para gipuzkoa

para potenciar la competitividad de la industria y del comercio del territorio y ayudar a la regeneración de la bahía el objetivo es que esta infraestructura contribuya en un uno coma cinco por ciento en el producto interior bruto anual del territorio

ser competitivas es decir gracias a esta futura infraestructura

a otros puertos que significa un aumento en los costes porque el puerto de pasaia es ya una empresa tractora del territorio y con su mejora se consolidaría el puerto exterior generará empleo y riqueza en el territorio el puerto exterior mejorará la calidad de vida del entorno y del territorio y sacar la actividad del puerto fuera de la bahía

guipuzcoanos el puerto exterior permitirá la incorporación de nuevos servicios a las empresas

y urbanístico el puerto exterior será un referente en el mundo portuario las infraestructuras y el desarrollo territorial esta infraestructura no solo es para gipuzkoa y euskadi

y con el puerto exterior seguirá siéndolo así el puerto exterior de pasaia se complementará con los puertos comerciales de bilbao y santander en una línea litoral de doscientos cincuenta kilómetros de largo estos tres puertos comerciales

y ahí tiene que estar bien colocado el puerto exterior de pasaia por todo esto señorías las instituciones competentes en el puerto de pasaia

sí al puerto exterior debemos de continuar considerando sin ninguna duda el puerto exterior de pasaia como un proyecto clave para todos los vascos muchas gracias

pasaia es el puerto de gipuzkoa entrada y salida estratégica de mercancías desde hace siglos y motor de la actividad económica de nuestro país

gipuzkoa necesita un puerto comercial adaptado a sus necesidades económicas y pasaialdea

que genere riqueza y que conviva con sus necesidades sociales pasaiako portuak pasaialdea eta gipuzkoaren aktibitate ekonomikoaren duen papera

de las dificultades para invertir en proyectos de gran coste pero también somos conscientes de que hoy es cuando tenemos que seguir apostando por pasaia

tampoco las recogidas en el master plan pero no podemos dejar de planificar los grandes proyectos de país sin pensar en el futuro

y en el futuro sean necesarios adaptándolos a la realidad de cada momento

abogamos para que continúe la tramitación iniciada para conocer su resolución la resolución a lo planteado en el plan director por la autoridad portuaria y también

que también nos citaba el señor maneiro en su presentación es el ministerio de fomento el competente para resolver sobre la viabilidad del puerto exterior y para ello es necesario conocer las conclusiones de la tramitación administrativa del plan director

abogamos igualmente por potenciar la actividad económica nuestra apuesta firme por el puerto pasaia con un paro de dieciocho coma uno por ciento y los municipios de pasaialdea superan la media de paro de gipuzkoa de un catorce coma ocho por ciento también la de euskadi de un dieciséis coma nueve por ciento en pasaia el mes de abril había mil trescientos cincuenta y ocho personas sin empleo

estamos ante un nuevo proceso con un enfoque territorial que deberá integrar puerto y municipios

necesitamos conciliar el plan de utilización de los espacios portuarios

y para ello es necesario el consenso político e institucional

somos líderes en logística del transporte en euskadi las empresas del sector de transporte y logística facturan

somos geográficamente el lugar de paso y junto a la junquera entrada a la península ibérica sufrimos el tráfico constante de personas y mercancías es verdad

no planteamos la regeneración únicamente a partir de la disposición de suelo portuario desafectado porque si realizamos

una imposible disociación entre regeneración y puerto exterior inviable el marco sobre el que construir el consenso institucional necesario

desde el partido nacionalista vasco entendemos que es necesario acometer la rehabilitación ambiental y urbana de pasaia y hacerla compatible con la actividad portuaria necesidad de reordenar el ámbito portuario y necesidad de reordenación urbana para ello son necesarios los consensos institucionales

ayuntamientos diputación gobierno vasco y ministerio de fomento y además apostamos por el puerto de pasaia porque es motor de la economía guipuzcoana y futuro para pasaialdea

mila esker presidente andrea arraltsade on guztiok buenas tardes pues es el enésimo

sobre el puerto de pasajes y su futuro al que asistimos en este parlamento y los argumentos son

compromiso compartido por todos de regeneración de la bahía análisis medioambiental y económico financiero para tomar decisiones con respecto a la construcción o no

mejor y regenerado la importancia del puerto de pasajes para la economía guipuzcoana y para la economía vasca la importancia también de las autopistas del mar en el transporte de mercancías

durante muchos años me atrevería a decir verdad señora consejera

en una de sus hipérboles mi querido y apreciado y respetado señor maneiro una de sus hipérboles

hay nuevos argumentos que confirman que demuestran la barbaridad el despropósito de la defensa

de la actitud de los franceses con respecto a cualquier infraestructura que se haga este lado de la muga

como argumento de autoridad lo que diga los franceses con respeto a una infraestructura que se construye en pasaia pues le puedo asegurar que

porque no hay ni una sola infraestructura ni una fíjese lo que le voy a decir

cualquier tipo de impulso de apoyo o de sonrisa por parte de las instituciones francesas por cierto instituciones francesas que construyen en la desembocadura del río bidasoa nada más y nada menos que en el humedal del txingudi un puerto deportivo que ahora encima quieren ampliar no pretenda dar lecciones a nosotros de respeto

los franceses a los que usted utiliza como argumento de autoridad y se lo digo

en cualquier caso y también por dejar clara muy brevemente la posición

de una manera sucinta apostamos

por el puerto de pasajes como infraestructura estratégica

de gipuzkoa apostamos por el puerto exterior en pasaia por su viabilidad futura y para hacer todo lo que esté en nuestra mano para que siga siendo motor económico de gipuzkoa y también de euskadi apostamos también por la regeneración urbana

y creemos que es compatible regenerar la bahía

de una dársena exterior creemos que es compatible y no tengo para olvidar cuando el ex lehendakari ibarretxe fue a inaugurar creo que algunos de los que estamos aquí asistimos a esa inauguración

un pabellón que había sido ganado a no recuerdo el nombre exactamente y por no equivocarme no lo voy a reproducir

a antiguas infraestructuras y con todo el boato y toda la pompa

damos respuesta a las demandas de los ciudadanos de los vecinos de pasaia bueno aquello quedo

pero algo de vergüenza nos debería de dar hablar de regeneración de pasaia en esta cámara algo de vergüenza nos debería de dar y algo de vergüenza de dar

y todos cruzamos en la chalupa de un lado a otro diciendo que esta vez sí

esta legislatura sí y aznar seguro que también lo ha hecho esta legislatura sí se va regenerar pasaia bueno año dos mil trece y no ha sucedido sobre el puerto exterior

esperar a conocer las conclusiones de la tramitación del plan director y del estudio del impacto medioambiental esperar a conocer las conclusiones

que nos den y nos aporten esos documentos yo he estado con la misma gente con la que se ha reunido usted señor maniero

y conozco los argumentos que dan profesionales liberales técnicos que están gente que me merece todo el respeto del mundo que están en contra desde punto de vista medioambiental y

todo el respeto del mundo pero tengo la sensación solo la sensación de que quienes hacemos política quienes estamos en instituciones nos debemos también a los documentos oficiales que emanan de las propias instituciones y que si hay procedimiento administrativo en marcha la mejor

es esperar a la tramitación de esos expedientes administrativos y que

y podremos adoptar las mejores decisiones políticas para intentar no equivocarnos otra cosa es que hay una intencionalidad política para utilizar

para arrimar el hombro a no sé qué sardinas políticas eso es otra cuestión

a nuestro juicio nos lleva a esperar a la tramitación definitiva y a las conclusiones que nos aporten esos documentos que por cierto no van a tardar demasiado

se hacen discursos sobre futuribles se habla de lo que va a ser el puerto de pasaia pero se obvia lo fundamental

porque no han cambiado las posiciones de ninguna de las formaciones no han cambiado las posiciones de quienes siguen defendiendo

pueda ocasionarse ni ha cambiado la posición de quienes defendemos que no es necesario lo único que en este momento paraliza el proyecto es que no hay dinero por mucho que se intente desligar ahora de la operación urbanística que estaba planeada o asociada al desarrollo de la dársena exterior a través de la recalificación de suelo que fue cedido gratuitamente

y que la autoridad portuaria mantiene como si fuera un terreno árido lleno en este caso de residuos y lleno en este caso de ruinas industriales porque la línea la visión y la apuesta de quienes están o de quienes estáis a favor del puerto exterior de pasaia

por desgracia todavía no hemos conseguido que cambie la posición política

la ecología a los pies de las necesidades económicas y generalmente de las necesidades económicas de unos pocos casi siempre los mismos que son quienes incluso en este contexto de crisis tan dura y tan feroz y antes hemos estado hablando largo y tendido en diferentes puntos

brutales y siguen ganando dinero a paladas y es que es exactamente eso para nosotros lo contrario de lo necesario de lo razonable de lo sostenible e incluso de lo justo porque es eso lo que se esconde detrás de la apuesta todavía hoy presente en algunos partidos por el puerto exterior de pasaia desde eh bildu sostenemos

y que respondía en todo caso a la construcción de macro infraestructuras aún a costa de nuestro medio natural y ejemplos hay muchos

a la colaboración público privada como bálsamo que superara todas las dificultades y esa colaboración público privada tan hipervalorada en esta comunidad es la misma que en el estado español ha sido utilizada para desmanes a los que parece que por fin la justicia intenta poner remedio porque en esa colaboración pública privada en esa

lo privado para la gestión o para el desarrollo de opciones y operaciones urbanísticas o de otro tipo o industriales el único que se beneficia es el poder empresarial y el único que pierde siempre y de manera casi casi ineludible diríamos es la ciudadanía que ve cómo se pierde su patrimonio cómo se deposita su patrimonio en manos terceras también hay un beneficiario y se ha dicho también antes aquellos

la colaboración público privada hace de las puertas giratorias todo un futuro de vida y son capaces de pasar

a un consejo de administración y eso es la génesis de todo este modelo que permitía seguir construyendo de manera ilimitada y que permitía poder hablar de progreso

fuera una maravilla porque a veces se olvida que en este país ya ha habido grandes proyectos

no ya como importantes sino como imprescindibles para el desarrollo futuro de nuestra comunidad es más se decía que sin esos proyectos estaríamos viviendo poco menos

y no voy a hablar de ningún proyecto nuclear pero es que me viene a la cabeza un proyecto que sí que tiene que ver más con este me viene a la cabeza lo que hace unas décadas se decía

en urdaibai en el estuario de urdaibai por fortuna no existe

pero de quién es la responsabilidad de esos discursos catastrofistas que nos dice que el progreso es devastar y que sino devastamos

cuando el tiempo demuestra que es falso probablemente

beneficio de cualquier cosa y a cualquier precio en definitiva para nosotros es ecologizar y humanizar la economía

economizar la ecología que es lo que se hace por desgracia cada vez más veces esa es la lógica de sostenibilidad que en euskal herria y en todo el planeta creemos que necesitamos para salir de esta espiral de locura y de amor por el cemento y del beneficio como decía acotado a unos pocos

pasaiako badiaren hirigintza birgaituz horrek ez du atzeratzerik onartzen esa es nuestra propuesta señora vaquero esa es la propuesta que mantiene eh bildu y es la propuesta la señora maribel vaquero sí si que pensaba que me había equivocado de

pues esa es la propuesta que ha defendido eh bildu en todo momento y es la propuesta que además conecta con lo que han defendido grupos

que ha presentado el grupo de upyd no sé si es una propuesta de pancarta no sé si le parece un aterrizaje adecuado para el eslogan redondo pero esa es la propuesta y es una propuesta que hace compatible la existencia de un puerto pero

más que de un aprovechamiento de una regeneración que vienen pidiendo y reclamando

los vecinos de la herrera y eso es algo bastante razonable es algo bastante lógico es algo bastante posible y es algo que desde luego encaja a la perfección con lo que los vecinos aquellos que parecen que van ser los destinatarios de nuestros grandes proyectos que van a beneficiar en tanto sus vidas están reclamando no más que eso

planteatutakoa y como decía eso que vamos a apoyar no es otra cosa que lo que se ha venido señalando en muchas ocasiones hoy lo ha traído upyd pero que desde el dos mil nueve esta cuestión viene apareciendo sistemáticamente yo diría que anualmente por lo que uno ha podido ver en el diario de sesiones antes también pero a partir de ahí anualmente y en parámetros similares que tiene que ver con el abandono definitivo del puerto exterior de pasaia por insostenible e innecesario con la apuesta por un puerto

y por un puerto mixto con relación con bilbao y baiona y eso nos parece especialmente importante porque esto venía recogido en las directrices de ordenación del territorio de mil novecientos noventa y ocho y no se han desarrollado no se ha desarrollado y aquí nos hemos pegado hemos discutido sobre si eran las adecuadas o no

ha obtenido desarrollo porque además creemos que le da sentido a esa construcción nacional de la que también a veces habla en esta cámara

por multiplicar y competir entre nosotros da sentido que entendamos que el puerto de bilbao y el puerto de baiona

pueden servirnos para mejorar nuestro país es un conjunto sin necesidad de tener que plantearnos una competencia

intraterritorial y este caso que es válido para los puertos también lo es para los aeropuertos

en esta cámara es en definitiva dar respuesta a la exigencia inaplazable de los y las vecinas de pasaia con especial atención a lo expresado como decía antes por los vecinos de la herrera en muchas ocasiones

sin atar esta a la suerte del puerto exterior de pasaia porque yo es verdad o quizás soy el único que no ha tenido la oportunidad ni de cruzar la bahía de pasaia en txalupa ni a nado como parece que ha hecho el señor egibar es más cuando ha hablado

el señor semper a mí lo único que me ha venido a la cabeza y he estado en el lugar pero lo único que me ha venido a la cabeza ha sido la canción de barricada de bahía de pasaia emboscada criminal pero no me parecía

como argumento dialéctico por eso he sufrido un pequeño cortocircuito en cualquier caso

lo que le quería decir y lo que quería decir para finalizar es que todo este debate intenta ocultar un fracaso y el fracaso es que toda la operación

de costa porque sobre todo esperaba y confiaba en que iba ha obtener un

vendiendo así una maravillosa gestión de quienes estuvieran en este caso en el gobierno porque habían gastado poco dinero de lo público

que esos suelos fueron hace treinta años públicos que se cedieron a la autoridad portuaria para que los empleara que hoy los tiene abandonados y que se niega devolverlos a sus legítimos

sí gracias presidenta efectivamente parece ser que tampoco en esta ocasión vamos a conseguir que una mayoría de parlamentarios voten lo que internamente piensan

hay que pararlo cuanto antes tampoco en esta ocasión vamos a poder conseguir que una mayoría de parlamentarios vote a favor del abandono de este proyecto a pesar de que es obvio y es una obviedad que hay una mayoría de ciudadanos guipuzcoanos y vascos que consideran que efectivamente

es un disparate ni siquiera en esta ocasión vamos a poder conseguir que haya una mayoría de parlamentarios que voten a favor del abandono de este proyecto

y ni siquiera en estas circunstancias el grupo parlamentario que apoya a este gobierno va a votar a favor de esta iniciativa perfectamente razonable

y apoyada por la inmensa sociedad por la inmensa parte de la sociedad vasca ciertamente upyd a veces defiende cosas en fin que

son difíciles de defender porque aunque las consideramos justas reconocemos que estamos claramente en minoría pero en este caso lo cierto es que hay una mayoría de parlamentarios incluidos semper y otros muchos

este proyecto de puerto exterior no tiene ningún sentido y tiene todos los argumentos en contra para que se pueda realizar creo sinceramente que es así lo que pasa que los partidos políticos también tienen algo de buques

reconocer errores pasados o incluso les cuesta cambiar de posición a pesar de que los tiempos cambian y deberíamos aprender de los errores cometidos

incluían en su programa electoral la defensa del puerto exterior de pasajes y si no me equivoco ya hay partido políticos que este asunto

porque es absolutamente indefendible tengo que anunciarles que esta va a ser la última vez en que upyd va a traer este asunto a este parlamento

en dos o tres ocasiones efectivamente cada grupo sabrá

allá cada cual y en el futuro que cada cual eche la vista hacia atrás y en fin observe qué es efectivamente lo que ha defendido es

que solo la falta de dinero y la situación económica haya hecho que no se hayan iniciado las obras para poner en marcha este disparate es triste

repetir errores se incide en ellos los partidos políticos parece que siguen equivocándose siguen equivocándose en lugar de reconocer errores cometidos en el pasado y tener la cintura suficiente para poder cambiar de posición se enrocan

y que echemos la vista atrás para comprobar qué es efectivamente lo que hemos hecho en euskadi y fuera de euskadi desde construir aeropuertos sin pasajeros a poner en marcha líneas de alta velocidad sin pasajeros aeropuertos sin aviones

se incide en el error y creo que ustedes están cometiendo un grave error

antes se defendían con más vehemencia algunos de los argumentos que hemos escuchado

con la boca más pequeña el grupo socialista que parece ser el más efusivo en defender este proyecto ya reconoce que el término estratégico y prioritario lo desechan es ciertamente interesante y si no me equivoco el portavoz socialista ha dicho que efectivamente ya no utilizan estratégico y prioritario y el grupo nacionalistas vascos viene a decir que tal vez ahora no se puede hacer en fin algo se mueve

razones medioambientales razones económicas razones sociales es un absoluto disparate tratar de poner en marcha un puerto exterior en pasajes para hacer competencia al puerto de bilbao esto es un disparate y el argumento de los franceses lo he puesto encima de la mesa pero es que se acumulan a otros muchos

económicas y sociales de todo tipo se dice que el actual puerto de pasaia se queda viejo efectivamente lo que habría que hacer es modernizarlo invertir en él en lugar de dejarlo morir que es lo que se ha hecho en los últimos años en lugar de proponer

económico y social se tenía que haber invertido en él y no se quiso hacer se chantajeó a la población se le dijo a la ciudadanía un chantaje argumental

fuera para poder regenerar la bahía se chantajeó se engañó y durante largos años no se han dado los pasos que eran necesarios para regenerar la bahía por lo tanto la regeneración integral de la bahía pasaitarra no ha avanzado

por la construcción del puerto exterior en fin

no es necesario esperar a lo que venga a decir el ministerio de medio ambiente creo que tenemos suficientes argumentos para que nosotros mismos digamos que no es necesario

no suficientemente exprimidas el puerto actual tiene sus propias ventajas que han sido señaladas por diferentes expertos por ejemplo que las faenas de carga y descarga se pueden realizar durante todo el año

independientemente del estado del mar por lo tanto hacer que funcione el puerto actual regenerar la bahía colaborar con los puertos de baiona y bilbao y no repetir

del pasado creo sinceramente que esto es lo mejor para todos esto es lo mejor para los pasaitarras para los guipuzcoanos y para los vascos esto es lo que hemos traído aquí

no saldrá seguramente no lo traeremos en el futuro pero en todo caso lo importante es que

no nos podemos olvidar nunca de los vecinos de errenteria

de bidebieta de herrera de antxo y de trintxerpe no podemos olvidar como estos

y que mediante la construcción del puerto exterior ganarán en calidad de vida podrán disponer de dársena y de embarcadores viven a un paso del mar pero la nmenos uno las vías del topo

se levantan como barreras infranqueables señor matute usted dice que los únicos beneficiarios del puerto exterior son las empresas estos que yo le he nombrado los sesenta mil vecinos de estos municipios

el reto que las instituciones deben de cumplir es abrir esa muralla

que los ciudadanos puedan llegar a la ribera y caminar por su perímetro

en resumen volcar la comarca sobre la bahía y que la lámina de agua llegue a cada núcleo en definitiva debemos de crear una revolución urbana y sabemos todos que esa revolución es inviable si no se realiza el puerto exterior la construcción de este puerto sería una de las inversiones más importantes de nuestro territorio a los que hay que añadir

como la plataforma de lezo gaintxurizketa las inversiones privadas los accesos al puerto tanto por carretera como por ferrocarril señorías el puerto exterior de pasaia es un proyecto clave señor maneiro

la palabra más importante que estratégico es clave con mayúsculas para todos los afectados para los guipuzcoanos y para todos los vascos en general

ninguno ha cambiado de opinión lo que sí nos preocupa es los mensajes que lanza el partido nacionalista vasco un mensaje no del todo claro sobre una posible fusión

que hace que las empresas del puerto de pasaia lo vean con inquietud

la realización de nuevas inversiones en el propio puerto las empresas y usuarios del puerto no esconden su gran preocupación por la situación de incertidumbre que atraviesan en estos momentos hace falta una voluntad política clara

de la actividad portuaria en pasaia y ustedes saben

la continuidad del puerto ya que los efectos de la caída de la actividad y la falta de inversiones inevitablemente están afectando al empleo de muchos guipuzcoanos y guipuzcoanas por eso el partido socialista

de mínimos con el partido nacionalista vasco muchísimas gracias eskerrik asko

y eh bildu en general

en esto y en todos los aspectos no sé qué miedo se puede tener porque aquel que es privado es

la gran mayoría de los ciudadanos y colaboración pública privada puede ser con una empresa grande con una empresa pequeña

es decir siempre lo llevamos a unas interpretaciones sobre capital

solamente mantienen ustedes nosotros opinamos que hay que crear riqueza para poder repartirla que si no se crea difícilmente se reparte

de la zona de la herrera y yo creo que en eso tendríamos que tener mucho debate

en madrid en relación con el gobierno de zapatero de unos presupuestos

aquella negociación se ponía a debate la regeneración de la bahía de pasaia y hablábamos de la desafección

que el puerto no necesitaba y es tal así

y le solicitó a la autoridad portuaria que si no utilizaba esos terrenos

en el cual el director de la autoridad portuaria indicó la innecesariedad de esos terrenos se emitió el informe el consejo de administración

lo avaló se remitió a madrid en enero del dos mil once pero tenemos la gran sorpresa de que en junio del dos mil doce el presidente de la autoridad portuaria

en nombre de un consejo de administración le dice al presidente del puerto del estado que no es necesario desafectar esos terrenos porque

y vinculaba la desafectación al puerto exterior y como habían cambiado los intereses políticos tal vez no fuera necesario desafectar esos terrenos y ahora está en un cajón la desafectación de los terrenos de la herrera eso fue el pacto que hicimos ustedes con el partido socialista por eso

y no exija lo que ustedes no fueron capaces de realizar a eso es lo que me refiero no tenga cuidado que nosotros seguiremos solicitando la desafección

simplemente contestar porque creo que lo merece por respeto parlamentario al señor maneiro se lo he dicho alguna vez y entiéndame la expresión porque se lo digo desde el máximo respeto y aprecio que sabe que le tengo políticamente hinchante es usted un hinchante porque

contar las veces que usted dice despropósito que utiliza otro tipo de palabras hiperbólicas absolutamente perdón

de tanto insistir no nos asusta sino que se pasa usted de rosca con lo cual deja de asustarnos sobre las maldades

pero luego dice y que parece brillante

que una mayoría de parlamentarios vote lo que internamente piensan o sea usted ya además es capaz de saber lo que pensamos internamente

sino que además usted ha llegado ya a saber lo que pensamos en nuestro fuero interno me parece magnífico

antes ha tenido usted la oportunidad de debatir con el señor basagoiti sobre una compañera suya sobre una gran jefa suya

quien hoy es martillo de herejes la señora díez no

con ese papel que hoy representa en la política nacional de martillo de herejes mire yo se lo voy a decir claramente señor maneiro y se lo he dicho en alguna otra ocasión

mi opinión particular como guipuzcoano como representante político de gipuzkoa que hace que intenta acertar en las decisiones que adopta y que las posiciones política que tiene gipuzkoa ha evolucionado con respecto al puerto de exterior de pasajes yo lo he dicho en muchas ocasiones

encima me echa en cara que no he dicho esto si lo he dicho en muchas ocasiones ha evolucionado

una de ellas es la crisis económica pero la crisis económica es de hace relativamente poco ha evolucionado porque hemos sido profundizando en información también

porque hay más gente profesional que se ha interesado por esta infraestructura

desde una posición contraria porque hasta hacer relativamente pocos años quienes se oponían a la construcción

en todos los momentos en euskadi y hoy se han sumado también a esa posición contraria gente que a mí particularmente a mí grupo parlamentario nos aporta más tranquilidad

en el pensamiento se lo recomiendo que haga ese ejercicio usted también y que incluso

con quienes discrepamos pueden tener parte de razón es muy sano se lo aseguro y eso lleva a que hoy para agarrarnos a la hora de tomar una decisión a información veraz lo más veraz posible

lo más útil posible queramos esperar a la tramitación de un documento tan importante como es el que está en estos momentos en el ministerio de medio ambiente y usted dice

nosotros ya si eso tomamos la decisión pues eso me parece una frivolidad señor maneiro una absoluta frivolidad y le digo una cosa

si de la tramitación de ese informe se desprende con rotundidad y con claridad que

es medioambientalmente inviable y económicamente inviable nosotros le tomaremos el relevo para traer a esta cámara una proposición no de ley en contra
del puerto de pasajes del puerto exterior por supuesto muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea les planteaba el señor zaballos que

afectados o personas que viven en la zona del puerto de pasaia a mí lo que

la autoridad portuaria juega un papel jaizkibia juega un papel ustedes han jugado un papel en el gobierno central y ustedes han jugado un papel en el gobierno vasco y sin embargo las condiciones de

usted y yo y el conjunto de la cámara entiendo como adecuado o digno no hay más que ver

en que estado de abandono mantienen los terrenos que todavía pertenecen a la autoridad portuaria para entender

escasamente incluso la nueva montaña que les han creado en los terrenos abandonados una montaña naturalmente artificial y que ha sido rellenada con lo que han sacado de la lonja pesquera esa es la realidad de la herrera entonces hablarnos de un proyecto que quieren construir a futuro que va a ser maravilloso cuando en el día a día soporta unas condiciones de indignidad

yo no voy a decir que sea sonrojante pero desde luego no es demasiado estimulante para quienes lo están sufriendo

no es demasiado estimulante y nos preguntaba

que qué miedo teníamos con la colaboración público privada yo creo que es bastante razonable el miedo que tenemos yo más que miedo diría que es preocupación y creo que es bastante razonable

país también en el estado español más pero en este país también se ha utilizado recursos públicos ponerlos en manos privadas y favorecer el enriquecimiento de esos sectores privados confiando en que a su vez esos retornaran parte de lo dado desde lo público

claramente cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros a la hora de entender el modelo económico y social

pero estoy convencido de que tampoco quieren ser diferentes a nosotros cuando les diga que el miedo que nos da el modelo de colaboración público privada tiene que ver por ejemplo con que nueve

por los donativos que daban al partido popular y que permitían los sobresueldos algunas de esas empresas están colaborando en este país en las obras y en el trazado de tren de alta velocidad como fomento de construcciones y contratas y como acbi

y que lo van por haber favorecido procesos de enriquecimiento y de empoderamiento de partidos políticos

ahora mismo en esta definición pues tendría que preocuparse es eso por lo que nos preocupamos no me parece

entender la preocupación de eh bildu y nos intentan decir que la operación del puerto exterior de pasaia nada tiene que ver con los terrenos que bueno son dos realidades análogas que son dos realidades que discurren en el tiempo

por qué no se hace entonces el puerto exterior por qué no se hace pues muy sencillo porque el dinero lo pensaban sacar de la recalificación

eran públicos hace treinta años se cedieron a la autoridad portuaria hace un montón de años hace más de cinco años que no tienen ningún uso y que están abandonados y generando miseria

y sin embargo no se plantean retornarlos a lo público se planteaban ponerlos

para así obtener los beneficios necesarios para poder construir la dársena exterior

no encuentran quien compre esos terrenos para poder hacer esas viviendas tan maravillosas y no encuentran el dinero

para poder acometer la dársena exterior y ese es el debate real por eso señalaba en la primera intervención

a qué modelo de sostenibilidad tenemos que aquí lo que estamos encontrándonos en todo caso es la oposición férrea

propia podrán compartir o no pero de sostenibilidad ambiental y otra lógica la suya que choca con la realidad y la realidad es que no tienen el dinero para hacerlo

no deja de resultarme chocante oída la intervención del representante del partido socialista que puedan firmar una transacción porque yo oía al representante del partido socialista cuando decía que el puerto exterior será que el puerto exterior dará que el puerto exterior será capaz de y yo

que le he oído y ha sido muy gráfica decía el puerto exterior será un referente en el mundo portuario

porque esta vez parece que nos viene dado que no haya quien este dispuesto
a invertir como no lo está nunca y así por lo menos no devastar más nuestro territorio eskerrik asko

gracias señora presidenta buenas tardes a todos como décimos en la parte expositiva de la iniciativa que

se remitió a esta cámara la recomendación dos barra dos mil trece del ararteko de fecha cinco de febrero

dicha recomendación versaba sobre la necesidad de garantizar la accesibilidad universal en aquellos edificios residenciales colectivos que dispongan de barreras arquitectónicas

nos parecía un tema importante recoger esta recomendación y desde aquí intentar instar a las distintas instituciones a adoptar medidas para que dicha recomendación pueda cumplirse y en realidad como recogemos en la exposición lo que dice la recomendación no es más que poner negro sobre blanco lo que es una realidad que muchas personas se ven obligadas a vivir confinadas aisladas en sus domicilios y la razón no es otra

en los que se encuentran esos domicilios cuentan con unos obstáculos físicos que les impiden salir de los mismos

y estas dificultades no solo existen en el ámbito privado en los domicilios particulares sino que también hay espacios públicos que todavía

eso creo que todos lo tenemos claro en los edificios públicos por supuesto porque no es de recibo que las instituciones públicas los poderes públicos

sean reales y efectivas no sean accesibles porque no es de recibo que una sociedad que quiera basarse en la igualdad de todos no garantice la accesibilidad de todas las personas y especialmente como decía aún más si cabe a los propios edificios públicos

referir más al ámbito privado porque como decía hay que garantizar que nadie pueda ser condenado a vivir enclaustrado en su domicilio porque por falta de voluntad o por impedimentos técnicos o económicos el edificio en el que se encuentre dicho domicilio tenga barreras arquitectónicas y por ello

que puedan favorecer esa igualdad real y permitir esa accesibilidad universal

de la necesidad de vivienda y entorno accesible de la necesidad de promover las condiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho a circular

nosotros hemos de reconocer aquí que existen dificultades de todo tipo legales es necesario dotarnos de instrumentos normativos adecuados técnicos porque la configuración de muchas edificaciones

no se pueda poner elementos de accesibilidad como ascensores en el edificio

y económicas por el costo elevado que en muchas ocasiones supone la eliminación de barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores sobre todo en la época actual de crisis pero debemos intentar desde las instituciones públicas salvar todas estas dificultades con relación a las legales hay que distinguir

dado que la normativa no puede ser aplicada retroactivamente salvo que se lleve a cabo una reforma integral del edificio esta ley

barra dos mil establece la obligatoriedad de garantizar la utilización de los accesos y comunicaciones en las construcciones de nueva edificación es decir todos aquellos edificios residenciales construidos a partir de la entrada en vigor deben tener garantizada la accesibilidad universal

en euskadi no existía esta regulación técnica que obligara a la accesibilidad universal y por ello muchos de los edificios construidos con anterioridad a dicha fecha tienen un importante número de barreras arquitectónicas según datos del propio gobierno vasco en euskadi existe un parque de viviendas formado por un un millón cuatro mil setecientos cuarenta cuya antigüedad supera los treinta y nueve años

casi el veinte por ciento de la población considera que es el edificio el origen de sus problemas de movilidad y según datos del eustat todavía en el año dos mil diez

la accesibilidad a la vivienda y al resto de los espacios privativos del inmueble y es necesario

de eliminar las barreras del parque ya edificado ello se puede conseguir en primer lugar con la voluntad mayoritaria de los propietarios ya que según la ley se precisan la mayoría de dos quintos para la colocación del ascensor

salva esta necesidad de acuerdo mayoritario es cierto pero a falta de acuerdo es la disponibilidad económica de la persona con discapacidad

en hacer posible la eliminación de las barreras arquitectónicas y ello señorías consideramos no debiera ser así

de que no hay intereses contrapuestos o de que se tenga disponibilidad económica suficiente debiera articularse fórmulas para garantizar esa accesibilidad a todos por otra parte la ley nos da posibilidades de intervenir en las edificaciones con problemas de accesibilidad

a través de estos planes y en uso de la previsión incluida en el artículo

pueden ordenar a las comunidades de propietarios la realización de obras dirigidas a garantizar los derechos de todas las personas a la accesibilidad

y otro instrumento sería la inspección técnica de las edificaciones para poder diagnosticar los problemas de accesibilidad y fijar las medidas para garantizar la misma y supeditar así la concesión de subvenciones para rehabilitación de los edificios

de las barreras arquitectónicas vemos por tanto que la legislación estatal y la autonómica permiten intervenir en aquellos edificios que tienen problemas de accesibilidad permite determinar la necesidad de ejecutar obras de mejoras

con el objetivo como decía de garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos y eso

en la enmienda de transacción que finalmente hemos firmado que desarrollemos esas posibilidades normativas que tenemos

y para solventar estas dificultades es necesario como decía que se concedan

pero sería conveniente que todas esas ayudas se subordinases al cumplimiento de la obligación de realizar esas obras

y eso también se establece así en la enmienda desde el gobierno vasco nosotros hemos de reconocer que se tienen instrumentos que se han puesto en marcha instrumentos para conseguir esto por una parte está el plan estratégico de la comunidad autónoma del país vasco de rehabilitación de edificios

dos mil trece entre cuyos objetivos estaba la extensión a todo el territorio elaborar una ley que dé cobertura a todo el territorio de la política de rehabilitación

así mismo el año pasado se aprobó el plan revive plan que estaba dirigido a que las comunidades de propietarios

pudieran hacerlo y a este plan se dotó con nueve millónes

en dicho plan se establecía expresamente que esos proyectos de intervención en el patrimonio edificado

entre otras siendo las actuaciones destinadas a garantizar el acceso de los edificios desde la vivienda pública eliminando peldaños para salvar desniveles una

va a tener continuidad en este gobierno en el plan renove para el que se han anunciado que se van a destinar catorce millónes de euros y es necesario también señorías unificar las medidas adoptadas en todos los municipios vizcaínos para facilitar la instalación de ascensores

normativas y facilidades técnicas y económicas que no dependan de la sensibilidad del gobierno municipal de turno que permita la ocupación de suelo público

de transacción con el grupo nacionalistas vascos y socialistas vascos y desde aquí

itxaso enmienda que trata de recoger tanto los planteamientos de la iniciativa original como los planteamientos de estos dos grupos que mejoraban dicha iniciativa original por ello desde aquí y para terminar

sus derechos y desde luego el derecho a la accesibilidad debe ser uno de los derechos que prioritariamente debe ser garantizado nada más muchas gracias

sí presidenta con su permiso desde el escaño para decir que la iniciativa que se presenta hoy aquí

se hace eco de una recomendación del ararteko sobre la necesidad de garantizar la accesibilidad universal en los edificios residenciales colectivos y por lo tanto no es muy objetable es perfectamente suscribible

si bien la transacción que hemos alcanzado algunos grupos

las condiciones para esa accesibilidad que se pretende no sé si llegará a garantizar la accesibilidad universal ese sería el propósito pero bueno en todo caso

y esperar que la transacción alcanzada dé sus frutos lo antes posible nada más y muchas gracias eskerrik asko

la iniciativa que hoy propone el grupo popular contenía inicialmente

y regeneración que incorporase los deberes de conservación de los edificios

instrucciones con criterios técnicos dirigidos a la seguridad y habitabilidad en relación con instalación de ascensores en los edificios ya existentes

en los que se combine la concesión de ayudas económicas con las intervenciones dirigidas a garantizar la accesibilidad se centra por tanto en un aspecto concreto de la accesibilidad sobre los problemas de esa naturaleza que se plantean en los edificios

se trata como digo de un aspecto parcial de la accesibilidad o lo que entendemos por accesibilidad

el transporte medios de comunicación o cualquier producto o servicio

autonomía personal en todos estos campos existe una buena accesibilidad cuando estas personas

pasa desapercibido para el resto de personas pero hay otro grupo de personas

y que saben reconocer cuándo se encuentran en un entorno accesible y para apreciar esta necesidad es adecuado percibir previamente la existencia de la problemática

algo de dinámico algo cambiante en el sentido que todas las personas podemos llegar a ser discapacitados en un momento determinado bien temporalmente por ejemplo cuando nos rompemos una pierna y es entonces el momento que detectamos los problemas de accesibilidad a los que he hecho referencia o bien lo somos definitivamente recordemos también que a lo largo de nuestra vida las capacidades y sobre todo a medida que vamos entrando en años

este sentido les voy a proponer un pequeño ejercicio imaginemos

por un momento perdemos la visión y que tenemos que proceder a la votación de esta iniciativa desde nuestros escaños se imaginan las dificultades con que nos vamos a encontrar para proceder a la votación

pasando por los relativos a la posible rectificación del sentido del voto en su caso

y es entonces cuando descubrimos que no hemos incorporado el lenguaje de signos en nuestros escaños algo de esto

tal y como se pone de manifiesto en las numerosas reclamaciones que justifican el informe del ararteko que ya ha sido explicado perfectamente por la señora llanos que se centra en la problemática como digo de los ascensores en los edificios de uso residencial colectivo

pero sin quitarle un ápice de su valor creemos que debiera hacer más énfasis en que la accesibilidad no es solo un derecho a usar la ciudad y los edificios

sino que también es una obligación legal de los propietarios la de conservar los edificios en condiciones de accesibilidad legalmente exigibles

o realizar las actuaciones pertinentes para mejorar la accesibilidad de estos edificios

o bien como copropietario de una comunidad comunidad en la que muchas veces como usuarios del edificio demandamos esta accesibilidad

también se establece esta obligación y sin embargo en su informe pasa como de puntillas

para incorporar como digo entre los deberes de conservación de los edificios relativos a la accesibilidad

con las herramientas previstas en la ley para el desarrollo si este se estima adecuado tenemos la ley veinte barra mil novecientos noventa y siete y el decreto sesenta y ocho barra dos mil

de los entornos urbanos espacios públicos edificaciones y sistemas de información y comunicación

incluso se ha elaborado por el gobierno una guía de aplicación de la normativa técnica de accesibilidad y recientemente se ha aprobado el decreto doscientos cuarenta y uno barra dos mil doce de veintiuno de noviembre por el que se regula

normativa al respecto existe en la comunidad autónoma tenemos un parque edificado residencial ya se ha indicado de más de un millón de viviendas de las cuales el treinta y dos por ciento tienes más de cincuenta años y otro treinta y nueve por ciento una antigüedad

tanto en materia de conservación propiamente dicha como de eficiencia energética y a lo efectos que hoy nos ocupa de accesibilidad por tanto

este decreto con esta ite también se pueden recoger aquellas determinaciones sobre eficiencia energética que usted hacía referencia la ite concluye con la emisión de un dictamen que se presentará en el ayuntamiento correspondiente

es elaborar con esta información y con otras que poseen los ayuntamientos

y su coordinación con los planes especiales de rehabilitación planes que en euskadi en los municipios

son aprobados por los propios ayuntamientos además tenemos otra herramienta normativa como son las ordenanzas municipales bien urbanísticas o específicas de accesibilidad que en muchos municipios también de nuestra comunidad

regular la instalación de ascensores los planes municipales de accesibilidad

la estrategia de intervención dirigida a la colocación de ascensores bien en áreas concretas en las que se

se propicia que la administración municipal pueda comprobar estos aspectos concretos si han sido ejecutados o no

puede ordenar su práctica o inclusive realizarlas con carácter subsidiario a costa del obligado pero es que además de incorporarse

pueden contribuir a resucitar la actividad y el empleo en el sector inmobiliario de este modo la rehabilitación servirá para dinamizar el sector de la construcción mejorar la calidad de vida de los usuarios de los edificios antiguos sean propietarios o no y

tal y como se contempla en el plan renove que el gobierno recientemente ha expuesto

en este parlamento la enmienda presentada por nuestro grupo

y demás instrumentos normativos para la rehabilitación y dos que en el régimen subvencionado

a aquellas actuaciones que supongan eliminación de los problemas de accesibilidad que se prime económicamente a aquellos propietarios que realicen

aspectos que se han incorporado al texto transaccional que hemos suscrito con los grupos popular y socialista y solicitando el apoyo